gracias presidenta buenas tardes nosotros proponíamos inicialmente a través de esta proposición no de ley que este parlamento pudiera instar al gobierno vasco a que cree un grupo de especialistas que asesore al ejecutivo para la elaboración y presentación

de un proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos en el país vasco tomando como referencia señalábamos inicialmente en esta iniciativa la ley francesa

aprobada que pensamos que es una buena ley y que sin duda va a marcar el camino de lo que deben hacer distintos países a partir de ahora y en el caso de españa

y seguramente en el futuro más o menos inmediato las diferentes comunidades autónomas se han presentado diversas iniciativas con respecto a este tema tanto en esta cámara en marzo de dos mil catorce como en el propio congreso

en las últimas semanas se ha aprobado por unanimidad una iniciativa una proposición no de ley que iba más o menos en la línea de lo que nosotros planteamos

presentamos a esta cámara hoy volvemos a traer este tema al parlamento vasco porque consideramos que sigue teniendo especial relevancia y ciertamente nos gustaría poder aprobar o al menos ese era nuestro objetivo original

a reducir el desperdicio de alimentos como a concienciar sobre el mismo al conjunto de la sociedad españa desecha al año unos siete coma siete millónes

dentro de la unión europea encontrándose españa entre el sexto y séptimo lugar

dentro de la unión europea el mayor porcentaje de desecho en los países ricos se produce dentro de los hogares

le sigue muy de cerca con el treinta y nueve por ciento mientras que restaurantes y servicios alimenticios

el cinco por ciento aunque la mayor parte del desecho de alimentos se lleva a cabo por parte de los hogares y los restaurantes no debemos dejar ningún flanco sin cubrir y eso incluye a los supermercados y grandes superficies que aunque no son los que más desechan

que más puedan necesitarlos es mucho más sencilla que por ejemplo desde

debemos implicar a todos los agentes que forman parte de la cadena alimentaria es cierto que se han implementado varios intentos por reducir

autonómico es cierto que hay una mayor conciencia social en relación a esta cuestión en los últimos tiempos pero también es cierto que los desperdicios no se han reducido en la medida que se debería y los bancos de alimentos siguen reclamando mucha más ayuda es decir queda todavía mucho por hacer

que se estima cada año van a parar a la basura en todo el mundo según la fao hay millónes de personas que sufren problemas de malnutrición

por darles un dato muy concreto se desperdicia

todas las personas hambrientas la pobreza sigue siendo una realidad también en euskadi el banco de alimentos de bizkaia en su última memoria señalaba claros incrementos de la pobreza real

mientras que en álava es del ocho coma dos por ciento y en gipuzkoa el cuatro coma siete por ciento la ley recientemente aprobada en francia una referencia no solamente para los vascos sino para el conjunto de los españoles y también para los estados miembros de la unión europea creo que definitivamente marca un camino de lo que debería hacerse francia así se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir a los supermercados

obligándolos en cambio a donarla a organizaciones de caridad y bancos de alimentos las grandes cadenas de supermercados no podrán tirar a la basura los alimentos en buen estado que estén cerca de su fecha de consumo las organizaciones caritativas podrán entregar a las personas sin recursos para alimentarse millónes de platos de comida gratis cada año la ley deriva de una campaña multitudinaria impulsada por compradores activistas que luchan contra la pobreza y aquellos al desperdicio de comida los activistas de la campaña francesa esperan poder convencer a la unión europea para que se adopten medidas similares

a los supermercados también se les impedirá que echen a perder la comida a propósito

hurga en la basura coma de sus contenedores los gerentes de los supermercados de cuatrocientos metros cuadrados o más tendrán que firmar contratos de donación con organizaciones de caridad de lo contrario sufrirán penalizaciones que incluyen multas de hasta setenta y cinco mil euros o dos años de cárcel

director de una cadena de bancos de alimentos francesa la ley

y simbólicamente muy importante en su opinión la moda creciente entre algunos supermercados que ya donaban comida se verá sustancialmente reforzada a esta ley los bancos de alimentos y las organizaciones de caridad estarán obligados a recolectar y a almacenar la comida en condiciones higiénicas adecuadas y a repartirlas según se dice con dignidad la ley simplifica la forma

directamente a los bancos de alimentos algo parecido

en españa y en euskadi como decía al principio durante las últimas semanas se han presentado al menos dos iniciativas de dos grupos diferentes

se debatió fue aprobada por unanimidad en fin creo que es algo positivo creo que es una razonable y creo que merece la aprobación de todos los grupos presentes en esta cámara valoramos muy positivamente las iniciativas que se han ido aprobando pero consideramos que es necesario ir un poco más allá creemos que además de las redes de colaboración y de la concienciación sería recomendable establecer

e incluso penalizasen el que puedan desecharse toneladas de alimentos por eso pedimos al gobierno vasco

la elaboración de una ley así hemos firmado una enmienda de transacción con el grupo socialista que dice lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a crear una red solidaria para el aprovechamiento de excedentes alimentarios en colaboración con las diputaciones forales

agentes económicos vinculados con la cadena alimentaria así como organizaciones integradas en la cadena de aprovechamiento de alimentos a fin de promover acuerdos de colaboración

a limitar las pérdidas y desperdicios de alimentos incrementar su aprovechamiento optimizar la cooperación social y reducir impactos ambientales proponemos también en el segundo punto que este parlamento inste al gobierno vasco a regular legalmente en euskadi el desperdicio de alimentos el aprovechamiento de excedentes

para el aprovechamiento de alimentos estableciendo un sistema de penalizaciones ante el posible incumplimiento de las obligaciones legales que fuesen establecidas regulación creo que en este caso también como en tantos otros querer es poder y depende del gobierno que efectivamente pudiera aprobarse una ley de estas características una ley que en fin no debería tener excesiva dificultad una ley sencilla pero que en todo caso pudiera

ser útil para lo que proponemos no tenemos a día de hoy ley nacional es posible que en los próximos meses se debata sobre la cuestión seguramente en su momento pero mientras tanto pensamos que sería interesante que euskadi pueda tener su propia ley para alcanzar esos objetivos señalados en la justificación y en la propia proposición de esta iniciativa nada más gracias al grupo socialista por firmar esta transaccional y a los grupos que finalmente vayan

señorías como ya se ha dicho efectivamente en el año dos mil catorce el grupo popular presentó una iniciativa en esta cámara solicitando al gobierno que elaborase una estrategia junto con el sector con las administraciones con eudel ayuntamientos diputaciones y

alimentario que elaborase una estrategia con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos y esto es así porque también teníamos un mandato de la comisión europea del año dos mil trece en la que instaba a los estados

a que se reduzca a la mitad el desperdicio de alimentos y solicitaba que cada estado miembro elaborase un plan de acción contra el desperdicio de alimentos

como también se ha dicho el gobierno de españa elaboró esa estrategia y nosotros trajimos a esta cámara esta iniciativa

instábamos al gobierno vasco a que en coordinación con las diputaciones forales ayuntamientos y los diferentes agentes de la cadena alimentaria desarrollaran acciones comunes que contribuyeran

que permitían limitar las pérdidas y desperdicios de alimentos incrementar su aprovechamiento optimizar la cooperación social y reducir impactos ambientales que es lo que ustedes parte de lo que ustedes dicen en su primer párrafo de la enmienda de transacción

párrafo de la enmienda de la enmienda de transacción que nos han presentado señorías en españa son casi

cada año pero de esos ocho millónes de toneladas de alimentos que se pierden cada año un ochenta y siete por ciento corresponden a restos de alimentos sobrantes de las comidas

desperdiciamos porque hacemos malas compras o mal organizada la compra o porque nos organizamos mal la despensa el frigorífico o el congelador eso es básicamente un ochenta y seis por ciento de los desperdicios de alimentos luego hay otro

desde la recolección en el campo de determinados productos hasta la transformación la elaboración y la venta que es

como la de francia porque nos ha explicado qué bondades tiene la ley de francia quiere que regulemos pero no nos ha dicho qué

las cadenas de supermercados en españa me atrevo a decir casi el cien por ciento pero de las del país vasco el cien por ciento de las cadenas alimentarias

tienen ya una cadena de distribución de aquellos alimentos que están a punto de caducar o que están ya no para estar en el punto de venta y eso y lo distribuyen a los comedores sociales a los bancos de alimentos y a ámbito social eso aquí se hace

en francia porque también le voy a decir que el sistema de bancos de alimentos que hay en españa

por lo tanto no estamos en las mismas condiciones que francia en ese aspecto por ejemplo entonces qué quiere regular quién inspira esta iniciativa de la ley cuál es el objetivo de esta

recoger los alimentos o hacer un negocio con los alimentos

eso me gustaría saber porque cada uno opina de una manera y sabemos que hay

dudas de lo que hay detrás de esta iniciativa muchas dudas nos habla de sanciones pero otros también nos hablan de tasas

no sé si nos aclara igual vemos la luz pero no vemos la luz creemos que donde hay que hacer importantísima es en el ámbito de la sensibilización al ciudadano a nosotros nosotros mismos de cómo organizar las compras

determinados productos que tienes un excedente eso lo hacen muchas organizaciones hoy en españa que ya

por ejemplo hispacoop que es una asociación de la confederación de cooperativas de usuarios y consumidores en su página

pero es que hay otras asociaciones y están haciendo una labor de sensibilización y lo que décimos nosotros en la iniciativa que aprobamos en su momento que ha hecho ya dos años de la aprobación de aquella iniciativa de la estrategia

qué dificultades tienen igual o no en algunos ámbitos dónde se genera un residuo que es difícil de gestionar pero

no lo sé es que no estamos en las mismas condiciones que francia por lo tanto

desde luego la comisión europea no dijo que se haga un tratamiento legal de esto no indicó eso no por lo tanto de verdad

porque se haga una ley en el gobierno de españa en todas las comunidades autónomas o nos demuestran la necesidad urgente o es difícil de entenderlo

si nos dejan votar por párrafos al primer párrafo de su iniciativa porque como le decía es parte de la enmienda de transacción que aprobamos en esta cámara se centra en un aspecto solo de aquella iniciativa pero eso ya lo aprobamos hace dos años con lo cual lo vamos a votar a favor

enmienda de transacción que han hecho en vez de poner que se regule

vamos a ver qué vamos a regular y cómo porque igual de ese quince por ciento de residuos que no corresponde

de los domicilios y comedores pequeños cómo se está tratando

me quedan dudas de la idoneidad de esta regulación y regular

primero habrá que hacer un tratamiento poner unos sistemas y ver si esto se puede tratar de una manera normalizada sin tener que hacer una ley porque va a traer esa ley tasas alguien lo va a hacer sanciones que no sé si

no sé no lo sé igual se hace un estudio y sale que efectivamente es necesaria la ley

razonable que se estudie la posibilidad de regular pero usted

superior al de esta cámara que le obliga a marcar la regulación de facto pues nosotros no colaboraremos en esa

sobre esta cuestión el treinta y uno de octubre del dos mil trece preguntamos al consejero de empleo y políticas sociales sobre excedentes alimentarios y sobre bancos de alimentos

en relación con la mejora del aprovechamiento social de los excedentes alimentarios nos decía que eran las diputaciones forales las que estaban haciendo una meritoria labor

dirigidas a reducir ese despilfarro alimentario por parte de los sectores productores y distribuidores

en diciembre del dos mil trece comparecieron a petición del grupo socialista en este parlamento representantes los presidentes de los tres bancos de alimentos de araba bizkaia y gipuzkoa nos contaban cómo atendían en torno a setenta mil personas anualmente y queda mes de sumaban mil personas más a su lista de beneficiarios

hasta el día de hoy han pasado más de dos años espero que no se sigan sumando esas mil personas a esas listas porque evidentemente queda demostrado que no dan abasto dijeron que los bancos de alimentos pueden paliar puntualmente los efectos del hambre pero no pueden suplir la labor de un gobierno

y una regulación que evite el despilfarro de productos defectuosos por parte de los supermercados y cadenas alimentarias y una mayor coordinación con las diputaciones forales y los servicios sociales de base de los ayuntamientos para garantizar el control del destino final de los productores que distribuyan

en el parlamento vasco en pleno celebrado en marzo del dos mil catorce se aprobó un acuerdo una propuesta original del

acuerdo transado entre los grupos nacionalistas populares vascos

y ayuntamientos y diferentes agentes de la cadena alimentaria desarrollasen acciones comunes que contribuyeran a modificar actitudes procedimientos

incrementar sus aprovechamientos optimizar la cooperación social y reducir impactos ambientales y se daban distintas acciones a abordar en torno a estos temas se hablaba de la investigación para reducir los desperdicios alimentarios en los distintos eslabones de la cadena alimentaria impulsar cadenas cortas de distribución alimentaria mas sostenibles y la creación de una red solidaria para el aprovechamiento de excedentes alimentarios

aprovechamiento de alimentos referente al cumplimiento de este acuerdo contestaba la consejera de desarrollo económico y

en julio del dos mil quince a una pregunta formulada por el señor barrio y

y el desperdicio de alimentos pues bueno que se habían impulsado determinadas medidas concretas en el desarrollo de las cadenas cortas de distribución y hacía referencia en concreto al programa de desarrollo rural dos mil quince dos mil veinte pero no daba más explicaciones quiero recordar también que en mayo del dos mil quince unas de las resoluciones aprobadas en el monográfico sobre la acción política del gobierno vasco en materia de medio ambiente que se aprobó en la comisión había una resolución la número veintinueve que decía que el parlamento vasco

a un cambio real de actitudes procedimientos de trabajo y sistemas de gestión de todos los agentes de la cadena alimentaria que permita limitar la pérdida y desperdicio de alimentos y reducir presiones ambientales

nuevamente en esta cámara hoy sobre esta cuestión y he explicado todo esto porque he estado leyendo el debate del pleno que se sustanció en el pleno

la iniciativa transada es decir hemos avanzado ya hacia la posibilidad

dentro de la comunidad autónoma vasca y dentro de nuestro ámbito competencial

yo no entiendo que el aprovechamiento de los

sea un negocio para enriquecerse yo entiendo que tiene que tener un fin para eso está el gobierno para establecer los términos legales

evidentemente y lo que sí que entiendo es que hasta la fecha de hoy no hemos avanzado nada en esta materia porque desde luego varias han sido las iniciativas y de momento lo que se ha hecho desde las instituciones vascas

no ha supuesto lo que lográbamos o lo que queremos alcanzar

bancos de alimentos y las organizaciones sociales hacen una gran labor a mi me consta he colaborado en varias campañas recogiendo alimentos pero de momento no

la pobreza y la exclusión social que son las consecuencias más dramáticas

y eso es así porque hoy hablábamos de la pobreza laboral pero es que hay muchísimas familias que bueno que están trabajando

reciben prestaciones sociales que es que no llegan a cubrir realmente ya sus necesidades básicas porque evidentemente la vida sube y

entre alimentarse la luz el agua y toda esta cuestión pues no llega y muchas veces pues la alimentación y los gastos propios

en nuestra enmienda que presentamos a la propuesta original nosotros eliminamos toda referencia a la ley francesa nosotros en nuestra enmienda el grupo socialistas vascos decíamos que

la federación de bancos de alimentos de euskadi agentes económicos vinculados con la cadena alimentaria así como organizaciones

de alimentos a fin de promover acuerdos de colaboración y actuaciones tendentes al aprovechamiento de alimentos y en segundo lugar pues instábamos a regular legalmente en la comunidad el aprovechamiento de los excedentes alimentarios y la constitución de esa cadena solidaria para el aprovechamiento yo creo que es una iniciativa

es una iniciativa nada descabellada y desde luego aquí queda muy claro lo que el grupo socialista cree que se tiene que hacer en esta materia y que desde luego

y de aquí a un tiempo vamos a ver como los estados miembros van a empezar a legislar

y respetando las posiciones del resto de grupos pues bueno sí que pediríamos que se apoyase esta enmienda de transacción eskerrik asko

solo que esta probablemente lo vamos a ver más veces porque esto es un problema

porque en el fondo esto es el resultado de una sociedad que lleva ya tiempo

y resulta muy difícil que le demos sin más una vuelta de ese comportamiento a la vez

que ayudan a generar una conciencia social de rechazo al despilfarro pero todavía tengo la sensación de que es un rechazo estético no hay todavía una toma de conciencia individual sobre el comportamiento el asunto de hoy deviene sobre el despilfarro de alimentos

que nuestra sociedad de blancos occidentales europeos se ha acostumbrado porque lo mismo que hay gente que ya ha aprendido a desglosar el despilfarro

la hemos generado su pobreza laboral energética alimentaria

otra cosa es que nos pongamos de acuerdo cual es el umbral económico de esa categoría en cambio el despilfarro ese sí que va por barrios el despilfarro

uno despilfarrador alimentario que lo somos casi todos seguro que hay alguien

no parece que es la mayoría centrados ya en el despilfarro alimentario deberíamos conocer qué perspectiva es el asunto tal

el informe del comité económico y social de la unión europea del dos mil trece todavía reciente

solo se puede analizar desde una perspectiva global ya se ha dicho aquí desde la cosecha hasta el consumo en toda la cadena hay que analizarlo globalmente no se puede

al mismo tiempo hay que analizarlo globalmente desde los impactos que genera y el informe habla de que el impacto más importante es el medioambiental

sobre todo en la parte precisamente en la que hablamos en gran medida de aprovechamiento que es la parte fermentable

que ese informe lo hace más en los términos de que se trata de un alarde lo dice textualmente un alarde éticamente insoportable bien

con la pnl que se había propuesto hoy cuál de los despilfarros pretendemos abordar todos

la parte medioambiental la parte social algún área

no voy a repetir las cifras todas que ya las di en el dos mil catorce y hoy se han dado pero sí quiero

y el cinco por ciento en la distribución el cinco por ciento y que entre todos los europeos desperdiciamos

echamos a la basura la quinta parte de lo que compramos diariamente la quinta parte el veinte por ciento esos son datos

una vez que he enmarcado esta multirrealidad vayamos al núcleo de la proposición presentada por el señor maneiro que trata sobre una posible solución una posible solución que no es otra que hacer una ley imitadora de la ley francesa recientemente aprobada pero claro analicemos esa ley

que está ocurriendo en francia con esa ley esa voluntariosa ley

incide sobre los responsables del cinco por ciento del desperdicio yo diría que de menos

es decir estaremos hablando del tres o el cuatro por ciento de la situación esta

un serio problema a los bancos de alimentos los bancos de alimentos no estaban preparados para la entrada masiva de está cantidad de productos no solo frescos

porque la ley les transfiere a los bancos la necesidad de la infraestructura y la logística es muy fácil para un supermercado decir hay tiene usted esto señorito banco

otro riesgo el riesgo alimentario el riesgo de la seguridad alimentaria de la salud alimentaria porque esos productos tienen que ir inmediatamente a los necesitados del banco de alimentos que no son precisamente los más saludables y claro les estamos dando un producto

para señalar la ley sí es cierto ha puesto en el frontispicio de la opinión pública el problema del desperdicio alimentario en ese sentido usted lo ha dicho

está muy bien desde el simbolismo pero qué realidad va a solucionar les ha puesto a los bancos de alimentos en la tesitura de invertir etcétera etcétera y todo ello por intentar solucionar el tres o el cuatro por ciento del problema porque realmente luego

no se soluciona con una lechuga remostada o una manzana desvaída hay que ir digamos hay que ser serios con estas cosas cuando el informe

sí habla de la posibilidad de que los supermercados colaboren pero que colaboren desde dar orientaciones al consumidor para que

para un montón de cosas y además dice que las autoridades deberían facilitar la entrega de alimentos a los bancos pero teniendo como prioridad la seguridad la seguridad que alimentaria no la seguridad de garantía de alimentos sino la safety

estamos pues hablando de un problema serio aplicándose aplicándoselo exclusivamente al responsable del cuatro o cinco por ciento del problema

y dejamos el serísimo problema medioambiental marginado con esta propuesta puede quedar muy bien en los titulares puede ser simbólicamente significativo en un momento pero no va a servir qué se pretende abordar realmente con esta proposición de ley

porque los dos a la vez no puede ser no es necesariamente así no puede ser se puede hacer algo para los dos pero no van necesariamente unidos

próxima lo que va a solucionar las cosas hay que

estoy seguro que hay más alimentos disponibles bajan los precios y hay más gente

en este sentido la transacción pactada y ahora ya voy a la transacción

nosotros habíamos presentado como enmienda por lo tanto si también si nos dejan botar por separado nosotros apoyaremos el primer punto no entiendo el segundo no entiendo el segundo porque es el mismo que el primero pero se haga una ley exactamente el mismo que el primero es decir en el primero dicen que el gobierno trabaje para hacer una red y en el segundo que se haga una ley para esa red pero además aclarando una cosa que si alguien no cumple pun multa eso es como caballo equino es una redundancia con ley es caballo equino con ley es así

no entiendo ese punto insistiré en que la responsabilidad está en toda la cadena en toda la cadena hay que trabajar en la sensibilización de toda la cadena y fundamentalmente en la sensibilización de los hogares que destrozan es cuarenta y dos por ciento de los residuos alimentarios que se generan en este país

piense en esa cantidad de pan que termina diariamente en la basura en esas ofertas de supermercado de dos por uno que normalmente el segundo termina podrido y también en la basura

en el que llenamos el plato nos comemos el veinte por ciento y además venimos con una indigestión a casa el ochenta por ciento termina en la basura si

filosofo francés del siglo dieciocho la sociedad está dividida en dos grandes clases los de los que tiene más comida

intentemos trabajar para sensibilizar para que unos disminuyan su acaparamiento de comida y los segundos puedan tener más acceso a ella pero no a punto de caducar

salvo los yogures para el ministro cañete que esos a él le sirven

enseñar mostrar y sensibilizar sobre la máxima de que debemos tratar de huir de opulencia ese es el gran debate

emocionalmente solidarios y conscientes de la escasez muchas gracias eskerrik asko telleria jauna

y también al resto de grupos que al menos van a votar el primero de los puntos este asunto no se lo ha inventado upyd este asunto ya fue debatido en esta cámara a iniciativa del grupo popular que efectivamente

un problema y que por lo tanto hay que poner en marcha una serie de actuaciones para

votó una transaccional el pasado día trece de marzo del año dos mil catorce el asunto parece ser que preocupa

popular por razones estas quizás sí sospechosas

es necesaria la articulación de una ley o no nosotros pensamos que sí nosotros pensamos que esa transaccional que todos nosotros firmamos ya

en marcha nosotros pensamos que estas medidas y algunas otras deberían tener forma legal

en una ley nacional o una ley autonómica como es el caso que proponemos

la verdad que todos ustedes han hecho reflexiones muy interesantes algunas de ellas

pero que en todo caso compartimos ciertamente los responsables somos todos fundamentalmente un asunto esencial es que compramos

y esto es cierto y alguien ha puesto o ha recordado la necesidad de que los bancos de alimentos tengan una infraestructura y una estrategia perfectamente diseñada para

asunto excesivamente nuevo y por lo tanto hay muchas cosas que corregir articular

de la ley evidentemente es fundamental y aquí se ha dicho por parte de todos la sensibilización de los hogares y de toda la cadena es importante huir de la opulencia

y estamos de acuerdo con todo esto pero mientras esto no se alcance pensamos que una ley que incluya determinadas medidas y sanciones incluidas

el despilfarro de alimentos en la medida de lo posible y mientras se produce este despilfarro de alimentos estos alimentos en buenas condiciones puedan llegar a quienes los necesitan creo que es muy sencillo de entender esto es básicamente lo que pretendemos regular

algunas de las cosas que en francia se ha pretendido regular como es prohibir a los supermercados que tiren o destruyan la comida

obligándolos en cambio a donarla a organizaciones de caridad y bancos de alimentos este sería uno de los objetivos se nos dice no pero esto ya se hace

para que haya una mayor seguridad jurídica y las cosas puedan hacerse bien a los supermercados también se les impedirá que echen a perder la comida a propósito una práctica habitual para evitar que la gente que urge en la basura coma de sus contenedores

en fin una serie de medidas no los bancos de alimentos y las organizaciones de caridad estarán obligados a recolectar y almacenar la comida

con dignidad también es una cosa que aquí se debería y perfectamente regular o por señalar algunas de las propuestas apuntadas por otros grupos recientemente en el congreso de los diputados y que recibieron el apoyo unánime de toda la cámara incorporar en ese proyecto de ley

y destinarlos a organizaciones sociales sin ánimo de lucro

de la pobreza comprender en esa ley medidas de reutilización y reciclaje

humano beneficiando así a la economía y al medioambiente obligar sí obligar efectivamente quizás sea este el problema y lo que a algunos les preocupa

a ser transparentes y hacer público el destino de los productos alimentarios

estas son algunos de los objetivos planteados incluso por otros grupos en el congreso y que han recibido el apoyo unánime creo que se entiende perfectamente reflejar en esta ley todas las exigencias de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y exigir que lo que supuestamente ya se hace efectivamente se controle que realmente se haga y exista seguridad jurídica y se haga perfectamente bien todo esto es lo que pretendemos si además está

y escrito en esa transaccional que hemos planteado en el segundo de los puntos se señala cuales son algunos de los objetivos de esta ley creo por lo tanto que se entiende perfectamente qué es lo que se propone

los estados miembro poco a poco se van a aprobar leyes

la referencia a la ley francesa por ser la primera pero

puede ser una buena referencia nosotros no tenemos ningún tipo de interés superior o sospechoso o que no pueda contarse nuestros intereses están perfectamente explicados en esa iniciativa quizás otros tengan otros intereses lo que creo que no se puede argumentar es

porque a los supermercados o determinadas corporaciones

muy flojo creo que hay mucho por hacer en este asunto y puesto que además en esta comunidad y en otras se hacen leyes para casi todo creo que este es asunto importante que puede merecer perfectamente
una ley y una buena ley gracias eskerrik asko maneiro jauna lópez de ocariz andrea

señor maneiro usted está en su cerrazón creo que la propuesta que le hemos hecho es estudiar la posibilidad de regular y usted

me sorprende que no sea usted capaz de modular con todas las dudas y abanicos que ha abierto aquí lo interesante lo lógico sería

la posibilidad de regular creo que es bastante lógico usted quiere regular que recoja eso el documento yo no sé cuáles son sus compromisos

por el que voy a apoyar al primer punto y porque el segundo punto me genera muchas dudas

por no aceptar una ley ha dicho que hay cuestiones sospechosas de que nosotros no queramos que se apruebe una ley le ha faltado esto para llamarme corrupto hombre ya está bien

aquí que salga una ley primero porque si usted quiere hacerla la hace y la presenta y punto no tengo que pedirle yo al gobierno que la haga segundo

pide en su punto que se regule legalmente el desperdicio de alimentos eso no es meterse ni con los supermercados ni con los hogares ni con nadie tal como está escrito aquí no dicen una ley que regule los supermercados tercero

cuarto porque puede haber mucha parte de la sociedad que en el momento que digamos a una ley

quinto porque a los supermercados les viene mucho mejor que les obliguen darlo a un banco de alimentos que les es gratis que darlo a un vertedero que les cuesta una pasta la tasa argumentos para pensar que no soy sospechoso de nada que no soy corrupto por no querer hacer una ley que controla los supermercados que usted es muy dado se le va enseguida la palabra y no puede ser

para acusar a los demás de que tenemos intereses ocultos no ya vale ya vale

en un tema menor como este trabajemos la sensibilización y no la legalización que además le hemos dicho que le aprobamos el primer punto aprobar el primero es aprobar el segundo si dice exactamente lo mismo le insisto caballo equino

vuelvo a repetir una cosa que dije en el debate del año dos mil catorce

cité y vuelvo a insistir cité que hay que trabajar

volvamos a lo que hacían nuestras madres que cogían lo que dejabas en el plato cada lunes cada martes cada miércoles cada jueves y cada viernes

de lo que había ahorrábamos llevar la materia orgánica al vertedero solucionamos el problema no teníamos que hacer atez ate iba muy poco a la basura éramos así todavía no éramos opulentos luego nos hicimos opulentos no sé por qué no sé si por las grandes corporaciones o porque nos volvimos locos todos pero no lo sé por cierto

a aquellas amas de casa que han ahorrado un montón de tiempo en el adelanto del cambio climático porque nos lo comíamos todo

era la manera de trasegar pero en cualquier caso es así y por tanto no piense que una ley

de solucionar el desperdicio de alimentos mire porque

que es lo que está ocurriendo en francia con gran bombo y platillo se señala un culpable

se señala un culpable que es el responsable del cinco por ciento y el resto de los ciudadanos

y lavándonos las manos muchas gracias eskerrik asko

carmelo barrio ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko sí buenas tardes gracias
presidenta yo no me voy a extender mucho en la presentación de esta proposición no de ley

los que hablamos y los que debatimos sobre economía social en la cámara pues lo conocemos no es un tema nuevo tampoco es una

una idea original del grupo al que represento arranca más de una ley del partido socialista en el congreso de los diputados aprobada por todos los grupos parlamentarios por unanimidad en el dos mil once o sea que es una

que tuvo un acuerdo importante y arranca también de la opinión de la doctrina vasca jurídica en materia de economía y derecho

jurídico política en materia de necesidades de fomento de la economía social en esta tierra por otro lado tierra y país señero y a la cabeza en regulaciones normativas y en regulaciones de formulas de gestión de economía social pues como todos ustedes conocen y proposición no de ley trataba de dar un paso más un paso más les aseguro se dará si no es en esta legislatura en la siguiente pero será algo que se

profundización en el catálogo de las entidades de la economía social y en lo que será un órgano definitivo en relación con la economía social

asesor y consultivo de las administraciones publicas en cualquier caso nosotros queríamos con el fin de progresar de incidir en el fomento de la economía social en euskadi

que el gobierno vasco junto con el sector hemos visto en esta legislatura pequeños desencuentros

nosotros seguimos tratando de tender puentes y además lo hemos hablado también con los profesores de las universidades

tejiendo complicidades sinergias no comunes con el sector por parte de las administraciones que se den los pasos necesarios

canales de actuación conocimiento y ordenación que sirvan para reforzar la presencia el desarrollo de esta forma de generación económica de la economía social y del empleo

ya salió de la ley cinco barra dos mil once y que se definió cuyo

es una ley importante una ley aprobada por los grupos parlamentarios en dos mil once con unanimidad queda todavía un camino por recorrer pero que nosotros también podemos hacerlo independientemente de que otros lo recorran o no esa ley

en las cortes generales da un importante ámbito un importante margen de maniobra a las comunidades autónomas en las funciones de fomento de actualización de economía social y desde luego

tenido a expertos universitarios que reconocieron y justificaron la necesidad de dar pasos importantes en relación con visibilidad esa necesidad de fomento de la economía social de sus formas de presencia y de sus formas de influencia socio económica en la sociedad de esa manera particular o especial de ser emprendedores

en relación con determinadas cuestiones que nosotros conocemos bien y que entroncan bien

en aquel momento vuelvo a decir por desarrollar y por dar pasos en su efectiva materialización nosotros

pues dos cuestiones la primera un poco más quizás compleja

para el fomento de la economía social la denominación

esa pero puede ser cualquier otra no ha habido otra denominaciones en otros sitios en relación con el fomento de la economía social que se configurara como un órgano asesor y consultivo de las

asesor consultivo importante potente porque además estaría instalado estaría anclado

con especificidades pero también con mucha historia y con mucho arraigo en estas fórmulas de generación

económica industrial productiva cooperativa etcétera y también en esa proposición no de ley hablábamos de instar al gobierno vasco

también en consonancia con la ley cinco barra dos mil once de la elaboración de ese catálogo de los diferentes tipos de economía

vasca que luego ese catálogo importante además activo actualizado

cinco barra dos mil once así lo requiere pero luego no cabe ninguna duda que va a ser productivo para

la visibilización para saber cómo está ese sector y para conocerlo de una manera efectiva y además perfectamente coordinado con las actividades y las actuaciones como luego me referire de ese consejo vasco de economía social

constructivo es un criterio constructivo es decir si la iniciativa no se aprueba no nos vamos a enfadar

como la ley de cooperativas no la vamos a tener en esta legislatura pero hay que hacerla porque es una necesidad imperiosa que se va a hacer es el fomento de la economía social y una de las bases es ese órgano importante básico porque sí que hay otros esfuerzos otros ámbitos donde la economía social está representada pero no con fuerza no con protagonismo propio

en otras actividades en otras necesidades es decir y ese momento de la economía social

y de creadores de empleo y de creadores de productividad de una manera específica nosotros hemos aprovechado y queremos aprovechar el más mínimo resquicio

para fomentar la economía en cualquiera de sus fórmulas nosotros también pensamos que esta es una fórmula hacerla en lo que es un sustento legal y además unas bases teóricas que aconsejan que se haga la economía social

ustedes y los que particularmente quienes han trabajo en este tema durante estas legislaturas sobre todo en estas dos últimas tiene aún un camino muy importante que recorrer es un instrumento de futuro

pero también tiene que desarrollar nuevas formas de reestructuración interna eso

y eso tendrá que darse nosotros presentamos una iniciativa parlamentaria una cuestión que ya hemos tratado

en este parlamento y que más tarde o temprano sin duda tendrá un desarrollo efectivo y adoptará una forma concreta institucionalizada y especializada

pero en cualquier caso eso sepan ustedes que en relación con la economía social y la economía solidaria se dará

la creación de un consejo vasco para el fomento de la economía social será un hecho sin duda y mi grupo quiere que ello se produzca cuanto antes

la conformación y elaboración actualizada de un catálogo de las entidades de la economía social vasca es un elemento importante a la hora de identificar sus modelos socio económicos de producción y de aplicarles normas

normas en relación con la economía social y otros acontecimientos que tienen que ver economía social los hemos vivido en estos últimos años los hemos vivido en el país vasco remontándonos a mil novecientos noventa y tres la ley de cooperativas

sus reformas la ley de sociedad cooperativa pequeña en dos mil ocho más reciente

de fomento de la economía social aprobada también en dos mil catorce por iniciativa del grupo juntero socialista una ley de referencia además en el ámbito

y sus trabajos además que han venido bien al gobierno en muchas ocasiones

ahora estamos con otro proyecto de ley en estudio

el proyecto de ley del tercer sector social economía pues bueno que también tiene que ver con estas cuestiones y el trabajo de los institutos cooperativos universitarios históricos de las tres universidades vascas no en este sentido y después la normativa española tenemos que

de economía social pero la ley trece barra dos mil trece de fomento integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de

la ley treinta y uno barra dos mil quince por la que se modifica la normativa de autoempleo y se adoptan medidas muy importantes de fomento y promoción del trabajo de autónomo y de la economía social que ha tenido que ver con las empresas de inserción de una manera

en relación con lo que tiene que ver estas cuestiones también la ley de dos mil quince de nueve de octubre de tercer sector de acción social también tercer sector

también en ese ámbito de economía que se discute o que se valora pero que está ahí

la ley también reciente cuarenta y cuatro barra dos mil quince de sociedades laborales

importantes en el ámbito estatal también en el ámbito vasco que nos hemos quedado un poco atrás con el proyecto de ley de cooperativas lamentablemente pero bueno podíamos haber avanzado

pero a pesar de que hay necesidades normativas pendientes de desarrollo en españa también aquí de actualización y de reforma también en euskadi

podemos seguir dando pasos y sobre todo en el desarrollo de normativas hemos escuchado el análisis de los expertos

política de los instrumentos a la que nosotros nos referimos en nuestra iniciativa y no es que tengamos prisa vuelvo a decir pero sí nos parece procedente que el gobierno pueda ir trabajando en su confección tenía como elementos cuestiones que ya nos plantearon

de derecho de las cooperativas de deusto de la propia universidad del país vasco

con ese consejo de fomento o se llame como se llame de la economía social en el país vasco como órgano asesor es decir sabemos que ese consejo debería de aglutinar a las administraciones no solamente a la administración autonomía a través de los representantes

correspondiente de empleo y servicios sociales en este caso o las diputaciones forales eudel también las entidades representativas de la economía social

universidades del propio observatorio vasco de economía social es que estamos bien preparados para crear un consejo aquí no iba a ser un chiringuito iba a ser un consejo de asesoramiento

y productividad es decir que en ese sentido yo creo que estábamos bien preparados y nos lo dijeron los expertos lo hemos visto como

y en ese sentido pues la ley el artículo trece de la ley cinco barra dos mil once

estatal pero dice la capacidad y la posibilidad que tienen las comunidades autónomas de encontrar una fórmula perfecta para articular esa cuestión también

reconfigurado esa posibilidad de actuación de un consejo de economía social pero sí que es cierto que es informar y colaborar en la elaboración de proyectos

elaborar informes en relación con esa cuestión evacuar cuando hay leyes cuando hay actualización del catálogo de las

realizar estudios e informes sobre cuestiones que afecten a la misma

y el respeto de los principios ordenadores de esas cuestiones y dar iniciativas y proponer iniciativas señorías yo creo que efectivamente es una propuesta que no es una propuesta original del grupo popular es una propuesta recogida de la legislación vigente por un lado y de las propuestas

institutos que informan en relación con esta cuestión vuelvo a decir

que se empiece a hacer en esta legislatura pero en cualquier caso yo creo que es importante tratarla y que

el sector de la economía social muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

mercantilización creciente tanto del ámbito público como del privado y la búsqueda del máximo beneficio económico la economía solidaria busca

consumo y financiación basadas en la justicia en la cooperación en la reciprocidad y en la ayuda mutua una economía que tiene en cuenta a las personas que pone en el centro a las personas al medio ambiente al desarrollo sostenible y sustentable que pone a las personas y el trabajo en el centro del sistema económico otorgando a los mercados

siempre al servicio del bienestar de todas las personas y de la reproducción de la vida y también de la sostenibilidad de nuestro entorno etekin ekonomikoa helburu

gracias presidenta buenas tardes

nuestro grupo no ha presentado enmienda porque va a declinar el ofrecimiento que nos hace el señor barrio en el día de hoy

en primer lugar y en la propia justificación que hace el proponente acude

cinco barra dos mil once de economía social recordar que esta es la primera ley de economía social que se

es decir cuando se desarrollan leyes a continuación en el derecho comparado siempre se pueden mejorar obviamente pero esta es la primera ley en el contexto europeo que se hace de economía social y como ha reconocido el señor barrio se hace bajo los auspicios de un gobierno socialista por lo tanto es también

para hacerlo con lo cual señor barrio está claro que su sensibilidad con la economía social no concuerda con la de su partido por lo menos esto es lo que parece

para la economía social bueno en primer lugar la ley ya define jurídicamente quiénes componen la economía social es decir y al establecer

qué tipo de entidades conforman la economía social obviamente ese es un concepto jurídico que no admite

como los que se han escuchado aquí que sí que pueden ser atendibles desde el punto de vista de la economía solidaria que es

más precisa pero en materia de economía social está claro qué entidades conforman esta economía social

claro nosotros entendemos que son entidades de muy diferente naturaleza

que aun siendo economía social qué asuntos en común puede tener una entidad de previsión social voluntaria con una cofradía de pescadores en principio poca porque como veremos a continuación todas ellas creemos que están bien y debidamente representadas institucionalmente y por qué lo digo ahora mismo ahora mismo las entidades de economía social están representadas en el ámbito vasco en los siguientes en los siguientes órganos consultivos en el consejo económico y social en el consejo vasco de servicios sociales en el consejo vasco de seguridad industrial en el consejo vasco para la inclusión social

en el consejo vasco de estadística en el instituto vasco de consumo en la comisión consultiva de consumo en el foro para la integración y participación de inmigrantes

en el consejo asesor de puertos en órgano consultivo de puertos y asuntos marítimos en el consejo consultivo de desarrollo rural

de manera que la economía social hoy por hoy entendemos que sí tiene una importante participación institucional en los órganos consultivos la tiene

claro desde el punto de vista de crear un órgano nuevo que ya lo contempla efectivamente la propia ley cinco barra dos mil once

no ha sido desarrollado por el gobierno es decir que ese consejo para el fomento tampoco ha tenido una articulación en fin conocida entendemos que aquí en el ámbito vasco las entidades que comprenden la economía social tienen

creemos que adecuada es posible como dice usted señor barrio en el futuro en el futuro un órgano de esa naturaleza pueda tener cabida

deslindar claramente qué son empresas de economía social o qué son por ejemplo como plantea euskal herria bildu esta tarde empresas de economía solidaria porque por ejemplo en francia

sí hizo una ley que se llamaba de economía social y solidaria claro cuando el concepto abarca digamos un universo mayor

entender que hay más entidades que pueden digamos formar parte del mismo claro hablan también del catálogo en materia de economía social no creemos que sea preciso catálogo aunque es verdad que los estudiosos y los académicos hablan de ello pero

quienes conforman esa economía social quienes la integran y aunque aparecen en diferentes ámbitos

y están sujetas a legislación estatal no así por ejemplo pasa pues

con las cooperativas que pueden funcionar con nuestra propia legislación entonces lo que nosotros creemos es que teniendo sensibilidad como cualquier otro grupo en materia de economía social lo demuestra el hecho de que esa ley fue auspiciada por los socialistas lo demostraría el hecho que voy a pasar por alto

el gobierno socialista en la comunidad autónoma y eso daría testimonio de que no es por falta de sensibilidad el hecho de rechazar en el día de hoy su propuesta señor barrio

la eficacia o la eficiencia o no daría digamos lugar a los objetivos que supuestamente usted porque sería un consejo en el que estarían entidades de muy diferente naturaleza que ahora sí tienen presencia en órganos consultivos que le son propios que le son propios y donde se desenvuelven formando parte de lo que es su propia actividad o su propia formulación jurídica dentro de lo que cabe de muy diferente tipo

esta es la razón no es que nos parezca una pretensión extraña lo que nos parece es que a día de hoy

la economía social concretamente en materia de los centros especiales de empleo todavía está esperando nuestro grupo a que el gobierno a punto de finalizar la legislatura

instale el dichoso registro para que las iniciativas de base social que quieran transformarse en centros especiales de empleo

así como la elaboración del catálogo en base a las capacidades de desarrollo que otorga la ley estatal cinco barra dos mil once de veintinueve de marzo para fomento de la economía social

yo no se si este consejo para fomento de la economía social se acabará haciendo

por nada pero nos está queriendo decir el señor barrio y mediante el señor barrio el grupo popular que el nuevo hito la nueva frontera para el fomento de la economía social en la comunidad autónoma vasca es la creación de este consejo vasco para fomento de la economía social y solo ese

pasa por la creación de un modelo que se ha dejado

en stand by y que duerme el sueño de los justos a nivel del estado

escuchamos que el consejo de fomento no se reunía desde hacía tres años máxime cuando tenemos un sector suficientemente institucionalizado si bien que es cierto por familias y

economía social hasta la fecha funciona razonablemente bien hay quien dirá que por que digo esto estoy haciendo un ejercicio de autocomplacencia yo creo que estoy describiendo la realidad también máxime cuando tenemos un grupo que por su acrónimo castellano responde al nombre de eges que en carta de respuesta a una petición de comparecencia que les hizo sus señorías respondieron diciendo que estaban en fase germinal y que no tenían nada que aportar y máxime cuando no se percibe ninguna necesidad ni ninguna inquietud en el sector más allá de interesentes aportaciones

mire señor barrio a menudo desde la política hablamos de la necesidad de economizar una serie de entes entidades y u organismos y yo creo que en esas economías tan importante como eliminar aquellas que no sirven no funcionan

es no crear nuevas basadas en la creación de necesidades artificiales por lo tanto nuestro grupo no estima necesario en el corto corto medio plazo

de la economía social en lo que respecta al catálogo bueno es una posición conocida que nuestro grupo no gusta demasiado la legislación básica del estado pero no se equivoquen no es que no nos guste porque sea legislación básica y del estado la aceptamos como reglas del juego

por la puerta de atrás pero nosotros cumplimos y cumpliremos con todas las normas y también con esta pero tenemos claro que lo que no vamos a hacer es instar al gobierno vasco a que haga los deberes que corresponde hacer a algún ministerio en madrid y me vendrán diciendo que

pero no léanse el tenor del artículo seis punto uno o sea seis párrafo primero de esta ley que traemos hoy a colación y que dice el ministerio de trabajo

elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de los diferentes tipos de entidades integrantes de la economía social teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente ley de forma coordinada

en cuanto a la información nosotros tenemos registros por familias de la economía social registros de cooperativas de sociedades laborales de mutualidades de fundaciones y asociaciones entre otros no sé si le parece suficiente a su señoría no sé si uniendo tales registros y por consiguiente la información contenida en todos ellos

pero en todo caso que cada palo aguante su vela señor barrio nosotros consideramos suficientes los registros existentes y si el ministerio de trabajo quiere elaborar un catálogo en base a lo estipulado por la ley que traccione del proyecto que lo trabaje que lo elabore y que nos indique qué información desea y cómo

una coordinación adecuada para una colaboración y para la información que sea precisa pero mientras tanto no vamos a instar al gobierno vasco a que haga los deberes que corresponde

el impulso de las actuaciones de promoción difusión y formación a la que se refiere el artículo ocho punto tres así como el funcionamiento del consejo para fomento de la economía social

tenga efectivamente disponibles para el ejercicio dos mil diez

conforme a lo establecido en el plan de acción inmediata para dos mil diez y para ejercicios sucesivos en el plan de austeridad de la administración general del estado dos mil once dos mil trece señorías

y en relación al artículo cuatro de la misma ley donde se establece como el primero de los principios orientadores de la economía social la primacía de las personas y el fin social sobre el capital

observando la evolución que se ha dado a la principal herramienta del que se dota esta ley que no es otra que el consejo para el fomento de la economía social creo que podríamos concluir que esta llamada

de fomento del postureo en torno a la economía social y en eso señor barrio hay que reconocerle que va usted por delante de todos pero

que me dispute el puesto cualquiera lamentablemente no ha sido usted usted se ha quedado por detrás absolutamente se ha quedado por detrás

hubiese tenido un aliado incondicional en el grupo popular y en este parlamentario en relación con esta cuestión

pero me hubiese gustado y yo les he querido ayudar en toda esta legislatura y a los socialistas en la legislatura pasada

yo haré lo que pueda y seguiré insistiendo le aseguro

este tema del consejo de la economía social le veremos al lehendakari no sé cuál será presidiendo el primero consejo de fomento de la economía social lo veremos y ese día se lo recordaré a usted señor urrutia y lo celebraremos lo recordaré y además le invitaré a lo que usted quiera tomar

estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho eh bildu

en relación con esta cuestión no vemos mal es decir es un debate un poco

la economía solidaria es economía social es así

el señor itxaso ha hecho referencia a la legislación francesa y bien

no nos cabe ninguna duda lamentablemente no lo podemos hacer ahora es difícil efectivamente ya definidas las entidades de economía social todavía ampliarlas un poco más en lo que no está tan definido que es en la economía solidaria pero bueno vuelvo a decir estamos trabajando en este parlamento

sector social como estamos trabajando estamos también

así que yo también me parece que es un poco raquítica la posición de la mayoría parlamentaria económica de este

y el partido nacionalista vasco en relación con una cuestión como esta que tiene que ver esencialmente con el empleo con la productividad con las fórmulas

y lamentablemente lo he visto

va a llegar nos queríamos anticipar un poco y que ese trabajo se hiciese

la primera ley de economía social la votamos la ley zapatero la votamos porque

en las cortes generales en relación con algo que era necesario definir la economía social sus entidades y las posibilidades de desarrollo también he reconocido que no se ha desarrollado lo suficiente aunque ha habido otros instrumentos de economía social aprobados en el congreso de los diputados durante la legislatura

nos hemos vanagloriado los vascos de que en economía social estábamos por delante de los demás

y ahora tenemos oportunidades de seguir y estamos perdiendo

esta quizá no sea la más relevante para nosotros es más importante la no presentación o

a ser posible aprobar en este parlamento la ley de cooperativas de euskadi que era necesaria

y eso hay que reconocerlo en esta legislatura hemos perdido posiciones y señor itxaso usted me dice dónde están

de economía social no se debaten cuestiones básicas es decir nosotros queríamos cuando hemos hablado de esa fórmula

que se concentrara y además que aglutinara precisamente a esas entidades que son bastante heterogéneas pero usted me dirá

no son heterogéneas las entidades independientemente de la fórmula societaria que adopten sociedades anónimas sociedades laborales pero

una cantera una acería o sea son fórmulas de producción distintas pues lo que pasa con las entidades de economía social son fórmulas de producción distintas pero en cualquier caso que es lo importante que son productividad que son generación de empleo

y llevarlo a un órgano definitivo porque efectivamente la economía social estará en quince consejos pero

en la mayoría de ellos con un carácter bastante residual o sea que en ese sentido

un cariz que desde luego no se ha dado hasta ahora y no me diga señor urrutia que el ministerio que

al lehendakari muchas veces y a la consejera de desarrollo económico euskadi tenemos que liderar políticas pues aquí no aquí nos estamos quedando por detrás

es una legislación del congreso de los diputados de las cortes generales pero nos daba una oportunidad de oro para avanzar desde luego el planteamiento que usted nos hace es un planteamiento raquítico es un planteamiento de retroceso y usted ha hecho mención a eges eges es una red es como un club privado que en este momento se está conformando

nosotros le hablábamos de un consejo institucional liderado por las instituciones con presencia de las instituciones y del sector y desde luego de fomento de acciones específicas para cosas como las que el señor itxaso nos pedía

ha incumplido en relación con las empresas de inserción pues un consejo como dios manda de fomento de la economía social hubiese tomado cartas en el asunto seguramente muchas gracias

el señor urrutia nos ha dicho que

enmienda que planteábamos como enmienda de adicción que no incorpora nada nuevo que no

de un mero término porque entendemos y es así que la economía solidaria

pero es verdad que entendemos que un consejo que aglutine

social y las que están dentro de la economía solidaria es necesario

porque saben y son conscientes de que juntos son más fuertes y de que

cada tipo de todas estas entidades

juntos pueden hacer más fuerza y crecer más y sensibilizar más a la sociedad

y por eso entendemos nosotros más allá lo he dicho en la primera intervención no apoyamos esta iniciativa que ha presentado hoy carmelo barrio porque estemos de acuerdo con la ley

creemos que tendría que ir más allá esa ley y que en muchos aspectos se queda corta que los principios indicadores tendrían que ir más allá y que más allá

esa ley se queda corta por eso he dicho que no es porque lo diga la ley es porque eh bildu cree que es necesario un consejo y un catálogo y no solamente eh bildu

los agentes que están dentro de este ámbito

por eso estamos de acuerdo con esta iniciativa y por eso vamos a apoyar nuestra enmienda que va más allá que la enmienda inicial y por eso pedimos al resto de grupos

bai arratsalde on berriro laburra izango naiz habla usted señor barrio de que

no sé si soy yo el apropiado para liderar esto también ha dicho que

creo que tampoco va a ser el caso dice que veremos a un lehendakari

inaugurando el consejo vasco de fomento pues ojalá y dice usted que lo celebraremos y que se pagará usted algo pues no será el único que se pague usted algo pero

hablando en serio esto de que no seguimos por delante de que vamos por detrás no

no vamos por detrás ni hemos perdido ninguna oportunidad creo que en esta comunidad precisamente en esta vamos por delante en materia de economía social que podríamos incorporar las terminologías que

y se podría reflexionar pero a mí entender no era exactamente eso sobre lo que tratábamos cada vez que hablamos de economía social señor barrio aprecio que tiene usted mucho deseo de hablar de la ley de cooperativas

ningún problema yo creo que es triste a mí también me produce tristeza el que no hayamos podido entrar

analizar la ley de cooperativas en este parlamento pero me da a mí que se ha practicado

y eso no es ni falta de idea ni falta de proyecto ni falta de liderazgo

me parece que únicamente es prudencia se reitera usted en la idea de que estamos por detrás por qué

por no aprobar hoy un consejo vasco para fomento de la economía social no yo creo que afortunadamente en materia de economía social como en otras pero en materia de economía y social estamos por delante y el hecho de que

este sector abarque el cuarenta y dos por ciento del empleo en la comunidad autónoma vasca

y subraya la importancia de disponer de diferentes opciones informativas como reflejo de la pluralidad instrumento para informar adecuadamente a la ciudadanía

de los medios de comunicación como intermediarios entre esta cámara y el resto de la sociedad a la que dan cuenta y ayudan a interpretar nuestras decisiones hiru